legebiltzarkideok egun on guztioi quiero empezar expresando

con los profesionales de los medios de comunicación tanto públicos como privados que en estos días están siendo despedidos y que se están movilizando para expresar su protesta

los socialistas defendamos la función social de los medios sean públicos para garantizar el derecho de la información plural que reside en los ciudadanos y que es ejecutada a través de profesionales que deben ejercer sus tareas libres

si nos preocupa que esta amenaza siga aunque alguno proclamen

nos preocupa aún más que su brazo ejecutor sea una empresa pública pagada con los impuestos de los ciudadanos que debe prestar un servicio público y que debe atender lo que este parlamento que representa a los ciudadanos le indica esta semana eusko irratia

y es posible que también lo haga el próximo domingo el mandato de esta dirección

y lo hace con un instrumento un ere que según han anunciado ya los propios afectados va a seguir el recorrido judicial por ello le preguntamos señora consejera qué va a hacer el gobierno para que la conflictividad instalada en la radio pública vasca

deje de afectar a la prestación de este servicio a los ciudadanos y ciudadanas eskerrik asko unzalu jauna

insiste usted en preguntar acerca del proceso de regularización de indefinidos no fijos de e i te be considero que ya hemos facilitado todas las explicaciones posibles al respecto tanto por escrito como mediante diversas intervenciones parlamentarias además de las facilitadas en el seno del consejo de administración del que usted es miembro

la inspección de la seguridad social requirió en dos mil nueve y dos mil diez la regularización de la situación de los empleados laboralizados

ustedes mismos estando en el gobierno anunciaron la necesidad de esta regularización en el año dos mil diez

un proceso que fue aprobado por mayoría cualitativa de dos tercios en el consejo de administración

no se negaron sino que votaron en blanco eskerrik asko uriarte

mire señora consejera escuche bien la pregunta yo no le he preguntado sobre el ere y todo lo que nos ha contado que ya nos lo ha repetido aquí varias veces le he preguntado concretamente

para acabar con la conflictividad en radio euskadi que está aparejando cambios y merma del servicio público eso es lo que le he preguntado

mire señora consejera este grupo parlamentario y este parlamentario

a comprender qué les pasa a ustedes qué razones tienen para penalizar para acosar de una manera tan rotunda y cruel a la radio pública

que emite en castellano y a los profesionales que la hacen en este caso ustedes el gobierno

en su conjunto se han inhibido totalmente del problema nosotros hemos procurado

hemos pedido al consejero de administración pública que adopte las mismas medidas en eusko irratia que él ha anunciado para la administración general solicitamos al consejero

que avalado por su historial negociador aplicara esas medidas negociadoras en el caso de eusko irratia y qué diferencia más abismal este señor consejero ha expresado hoy en respuesta a la primera pregunta en este pleno enfatizando en su capacidad de negociación y cómo ha sido capaz de

eso es lo que le estamos pidiendo señora consejera que actúe de esa manera que entre usted a actuar

como lo hacen en otras ocasiones eso es lo que le estamos pidiendo

eso no le estoy pidiendo es evidente señora consejera

es incapaz de negociar es incapaz de llegar a acuerdos por eso le solicitamos que usted como máxima responsable de este ente porque su departamento es

responsable del ente de radio televisión vasca que actúe que usted

que haga que eusko irratia emita libremente y le pido señora consejera

no creo que es lo más importante a veces ezaugarri horiek dituen erakunde bat kudeatzeak

errespetatu egin behar dira en todo caso es evidente que se trata de un proceso complejo y delicado que entraña inevitablemente una situación de alegría para los que se incorporan al proyecto

por ello se ha establecido un calendario de actuación del que se ha informado en el último consejo de administración que contemplan la aplicación de un protocolo de acogida y también de salida con el objetivo de atender no solo los aspectos formales sino también los personales

la gestión de un ente público como e i te be conlleva también otros aspectos más positivos que también conviene recordar

como por ejemplo en relación a la cuestión que nos ocupa el hecho de que el tribunal superior de justicia del país vasco haya avalado este proceso o en otro orden de cosas pero también importante el hecho de que euskadi irratia haya obtenido sus mejores niveles de audiencia

dos noticias interesantes y positivas para el grupo e i te be y en esta labor de intentar

y eliminar la conflictividad yo creo que no solamente es parte de la administración sino de todas las personas implicadas

gracias de nuevo presidenta buenos días señorías bien consejera

tiene un mandato simple simple simple la restricción inmediata y sustitución definitiva de las pelotas de goma como material antidisturbios en la ertzaintza para evitar

en la labor de los agentes y también se le exige que forme a estos en el manejo de los nuevos instrumentos antidisturbios para garantizar su seguridad y la de los ciudadanos

cautela seguridad y eficacia para atender esas situaciones violentas que exigen intervención policial principios que solamente

pero aprobados por todo el resto de los grupos parlamentarios incluido el que apoya al gobierno y eso es lo que figura en las actas del pleno del dieciséis de abril pero resulta que tres semanas después el seis de mayo

no es partidario de que se dé curso a este mandato parlamentario el director de la ertzaintza es un cargo nombrado expresamente por usted a sus expresas órdenes yo no quiero pensar consejera que va a desatender usted lo que con el voto del propio lehendakari se aprueba en esta cámara y además estoy convencida de que usted también está interesada en que se cumplan los principios que le he señalado cautela seguridad

cuándo se va a proceder a la sustitución definitiva de las pelotas de goma como material antidisturbios tal y como le exige este parlamento

gallastegui fíjese tengo la impresión de que la excusa de las declaraciones del director

le han venido a usted como anillo al dedo está tergiversando o por lo menos sacando de contexto esas declaraciones y utilizándolas parcialmente

pero que optó por quedarse con la palabra restricción y sustitución ya he dicho anteriormente en una pregunta que me ha formulado el señor maneiro que estamos en ello señora gallastegui pero le aseguro que no solamente en ello estamos cumpliendo con otros objetivos y decisiones estratégicas que quizás en verdad son más firmes y profundas que la simple sustitución de un material por otro

de sus técnicas de sus tácticas y de la preparación de los operativos de intervención

de violencia por complejas que estas sean para garantizar el máximo la seguridad de la ciudadanía y también la de los propios agentes eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

gracias señora presidenta vamos a ver señora consejera no es una cuestión de

contundencia o no es una cuestión de que ustedes tienen que cumplir los mandatos parlamentarios y lo que le estoy diciendo es que el director de la ertzaintza

tranquilamente dice que no es partidario de cumplirlos y lo que le estamos preguntando es si usted

o no porque con independencia de que lo sea o no el gobierno está obligado a cumplir los mandatos parlamentarios es así de sencillo luego no me ha dicho nada más efectivamente nosotros le décimos que hay eliminar de la ertzaintza y eso incluye la brigada móvil los

y que de hecho estarían ya desaparecidos si el gobierno socialista hubiera seguido gobernando

señora consejera es que lo hagan porque el texto que se aprobó en este parlamento lo que dice exactamente es que desaparezcan los lanza pelotas actuales

incluye a todas las brigadas nosolo la seguridad ciudadana

de sustituir ese sistema antidisturbios que no es el objeto

o no usted y su gobierno el mandato parlamentario ustedes van o no van a hacerlo y van a quitar

este material el problema es el director de la ertzaintza es quién va a dirigir las líneas de actuación deldepartamento

el que va a decidir si este gobierno cumple o no cumple con los mandatos parlamentarios en definitiva consejera la pregunta es muy sencilla es tan simple como el propio mandato

porque de eso estamos en ello qué significa cuando además usted ya ha adelantado

acuerdo hoy he oído dos interpretaciones diferentes igual tienen que aclararse ustedes qué es lo que quieren trasladar con el acuerdo en cualquier caso señora gallastegui ustedes regularon el uso del lanza pelotas e iniciaron el expediente de compra

les llevó más de año y medio entre la adquisición de las primeras unidades

habla en su exposición de que formaron

la hemos realizado en esta legislatura y consecuentemente también ha sido en esta legislatura cuando se ha procedido a la eliminación de los lanza pelotas

a su sustitución por los lanza bolas y a la restricción de uso de las lanza pelotas exclusivamente a las unidades especiales

se atreve a decir además que en esta legislatura no ha detectado ningún avance como si el único avance posible fuera el de la sustitución de un arma por otra pero no se ha preocupado de escuchar al director

aunque hoy le haya servido de excusa para este debate hoy gracias gracias a las decisiones

horizonte dos mil dieciséis tenemos una policía integral mejor dotada mejor ensamblada en nuestra realidad social los y las agentes de la brigada móvil cuentan

antitrauma adecuados para afrontar situaciones complejas los lanza bolas ya

por los propios agentes tenemos una instrucción de uso bien definida no se imparte formación sobre los lanza pelotas

unidades que ahora mismo excepcionalmente podrían utilizarla por tanto su uso está absolutamente prohibido fuera del ámbito de restricción

en definitiva la sustitución de los lanza pelotas

más una contribución más a la concepción de una policía mejor preparada

a la situación que vive euskadi estamos por tanto señora gallastegui mucho más cerca de lo que plantea esa proposición parlamentaria que

xabat moran marina sagastizabal ainhoa villaverde y bergoi madernaz fueron arrestados el seis de mayo por la ertzaintza

no había riesgo de fuga por esos sus familiares han interpuesto cuatro denuncias por detención ilegal ante los juzgados de gasteiz y bilbo repito no había riesgo de fuga el motivo de que la ertzaintza adelante ilegítimamente esta detención es claro no tiene métodos razonables ante los actos de desobediencia pacífica en protesta por estas detenciones lo demostró claramente

herri harresia en la que cientos de personas mostraron su solidaridad activa pero pacífica

igarki robles e ibon esteban realmente señora consejera le pareció adecuada proporcional congruente

a pocos metros a escasos metros de aquí está orgullosa de esa operación eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko

bizkar la orden de la audiencia nacional era clara localización notificación de la sentencia

de su ingreso en prisión provisional y efectivamente cuatro de las personas reclamadas por la justicia fueron localizadas se les comunicó la sentencia

otras dos consiguieron eludir la detención inmediatamente pusieron en marcha la maquinaria para su detención y buscar el enfrentamiento con la ertzaintza esa es la realidad

no es cometido de la ertzaintza prejuzgar las sentencias ni las órdenes judiciales

si la persona en cuestión no hubiera tenido interés explícito en ser detenido por la ertzaintza la ertzaintza antes de

invitó a los presentes a evitar cualquier situación que complicara las detenciones y las personas objeto de la detención tuvieron todas las oportunidades que quisieron

menos dramatizada menos coreada menos utilizada como

y deseo político unos lo hicieron verdad pero otros optaron por lo que ya es sobradamente conocido antifaces pelucas pinturas cuerdas cadenas todo lo que se les ocurrió en esas reuniones preparatorias y bien acompañados de gritos insultos y agresiones también a la ertzaintza una resistencia activa

pero pacífica no se lo dije una vez y se lo digo otra vez desde esta no vale predicar la insumisión para otros y ser insumiso uno mismo porque dígame qué policía

una policía desobediente que actúe al margen de la ley solo cuando usted le conviene eskerrik asko beltrán de heredia andrea

un vecino al que la ertzaintza no dejaba asistir a los heridos que estaba causando el operativo

enfadado tengo derecho a indignarme tengo derecho a indignarme compartimos esa indignación compartimos esa sensación tenemos derecho a indignarnos ante la actuación de la ertzaintza el origen del operativo era ilegítimo esa decisión de la audiencia nacional la detención de moran sagastizabal villaverde y madernaz fue ilegal y el ataque ante la actitud pacífica de la herri

absolutamente inadecuado desproporcionado cualquiera que tenga una mínima sensibilidad lo ve así señora consejera

es esta la ertzaintza para la convivencia objetivo de esa iniciativa del plan de paz es

le he dicho antes fue toda una liturgia

el acto electoral curiosamente mucha resistencia personas encadenadas la primera detenida hubo que llevarla encadenada a otras siete personas porque no era posible soltar abrir las cadenas en el sitio y no se podía prolongar más la detención pero mire curiosamente llegar a comisaría

la solución el desencadenamiento sencillo inmediato la liturgia ya había acabado llenaron la plaza de camisetas naranjas de pañuelos naranjas

en esa utilización electoral electoral del acto pero como digo una vez acabada esa liturgia cumplieron todos con la ley

hay cosas que parece que no han cambiado o que algunos no han evolucionado buscar el enfrentamiento constante con la ertzaintza y le he dicho antes insumisión sí pero para otros

cumplir con la ley sí cuando no hay cámaras esa es la realidad del acto que buscaban eskerrik asko beltrán de heredia andrea

cuando consideren oportuno tendrán la posibilidad de formular propuestas de alta médica dirigidas a la inspección médica de los servicios públicos de salud otro cambio importante en la inspección médica de los servicios públicos de salud deberá comunicar a la mutua y al inss en un plazo máximo de cinco días hábiles

en el caso de que el servicio público de salud desestime la propuesta de la mutua o no conteste en forma y plazo

que deberá contestar en un plazo de cuatro días eta beste aldaketa

iraungiko da y las mutuas también tendrán derecho al acceso al historial clínico de los trabajadores y trabajadoras

estándar por patologías tal y como ya lo hacen o como ya funcionan las mutuas para que tengan de orientación para dar las altas y estos son solo algunos de los cambios que supone esta reforma

que a pesar de que parecen únicamente algunos cambios técnicos son cambios de calado

de toda la sociedad en general y a la salud de los trabajadores y trabajadoras en particular erreformaren motibazioan absentismoaren tasa jaisteko

la ley trece barra dos mil catorce de veintiséis de diciembre por la que se modifica el texto refundido

y enfermedades profesionales de la seguridad social popularmente conocida como ley de mutuas a la que se refiere en su interpelación

y por lo tanto legislación básica el texto modifica una parte concreta del texto refundido a la ley general de la seguridad social aprobado por el real decreto legislativo

con la seguridad social el apartado uno de su artículo único dicta las modificaciones en la definición de las mutuas en su objeto constitución régimen económico financiero órganos de gobierno y participación patrimonio régimen de contratación su disolución y liquidación

de la ley general de seguridad social queda igual nada de lo expuesto

el apartado uno en su artículo único que es lo que constituye

afecta a los sistemas públicos de salud aipatu duzun legeak

el texto como usted bien ha definido en su artículo único tiene un apartado segundo que modifica la disposición

la que regula la gestión por las mutuas de la prestación económica por incapacidad temporal

pero efectivamente su contenido afecta a las funciones que los sistemas de salud públicos llevamos a cabo en la gestión de la incapacidad temporal

a partir de ahora por tanto lo que expondré a hacer referencia exclusivamente a este apartado segundo del artículo único de la ley treinta y cinco barra dos mil catorce que modifica la disposición adicional

las modificaciones principales de este texto que afecta a los servicios públicos son las siguientes

la respuesta a las propuestas de alta de las mutuas deberán producirse en un planto de tiempos sustancialmente más corto como usted bien ha referido un máximo de cinco días a partir del siguiente de la recepción de la propuesta de alta además dicha respuesta deberá ser comunicada

de salud no estima la propuesta de alta o no responde en el plazo establecido la mutua

de cuatro días segunda modificación las comunicaciones del sistema público de salud por un lado y el inss y la mutua por otro deberán realizarse preferentemente por medios

tercera modificación las mutuas pasan a poder realizar pruebas diagnósticas y tratamientos con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores adscritos a ellas

del médico del sistema público de salud y con el consentimiento del trabajador o trabajadora los resultados de estas pruebas y tratamientos

que asistan al trabajador para su incorporación a su historia clínica cuarta modificación las mutuas podrán firmar convenios

para realizar reconocimientos médicos pruebas diagnósticas informes tratamientos incluido intervenciones quirúrgicas etcétera que los servicios de salud soliciten para ello fijarán compensaciones económicas que los servicios de salud públicos habrán de satisfacer a las mutuas como compensación por los servicios prestados

en varias ocasiones nuestro criterio y también lo ha manifestado

acortar el plazo de respuesta a las propuestas de las mutuas estimamos que puede conllevar una disminución del número de respuestas dentro de los plazos por parte del sistema sanitario público y consecuentemente un aumento de solicitudes de alta de las mutuas

y por lo tanto no estamos de acuerdo osasun sistema publikoaren ezezko erantzuna jaso arte ezin izango da altaren proposamena

una derivación de las resoluciones sobre propuestas de alta desde los servicios públicos de salud en este caso osakidetza al ámbito

prozeduran por lo tanto consideramos conveniente y así lo vamos a hacer tomar actuaciones con el objeto de que el servicio público de salud

de manera que sigamos siendo el pronunciamiento del servicio público de salud el preeminente en el procedimiento de resolución de las propuestas de alta de las mutuas

en la comunicación entre profesores sanitarios de los servicios públicos de salud

para nosotros es un aspecto positivo pues entendemos que mejorará la atención al trabajador o trabajadora en incapacidad temporal derivada de contingencia común en cuanto a la organización de pruebas diagnósticas o tratamientos a un trabajador o trabajadora

entendemos que si se dispone del consentimiento del trabajador obligado y el procedimiento en cuestión se lleva a cabo a cuenta de los fondos propios de la mutua poco tenemos que decir desde el departamento de salud porque entendemos

será agilizar el procedimiento diagnóstico además

y tratamientos llevados a cabo en las mutuas se debe poner y se pondrá a disposición y

de los facultativos del sistema público de salud por lo cual solamente puede redundar en una asistencia sanitaria más ágil y por tanto de mayor calidad en beneficio del paciente

ya hemos manifestado en repetidas ocasiones que la modificación legislativa no nos gusta eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

muy claro si bien el señor darpón ha dicho que va a realizar algunas actuaciones que llevarán algunas actuaciones no me ha quedado muy claro cuáles van a ser

actuaciones para contestar en plazo eso supone que se van a contratar más personas porque evidentemente claro si con el mismo personal se va

cuantificar en cuanto el tiempo o el trabajo de las personas tanto de la inspección médica como de

requerimientos por parte de las mutuas y todos los informes que van a tener que contestar no sé si eso va a suponer la contratación

para estas tareas por otra parte también en cuanto a las pruebas diagnósticas que se van a poder realizar en

en las mutuas no sé si luego también pagaran por parte

es una de las denuncias que se hacen por parte

a la sanidad privada parte de todas esas pruebas también en las contingencias comunes

internacional de la salud laboral todos los sindicatos salieron a la calle y todos coincidieron en diferentes actos y movilizaciones

denunciar la ley de mutuas porque entre otras supone el recorte de la salud laboral los trabajadores y trabajadoras

a la privatización del sistema público de salud y desde eh bildu también queremos denunciar esta ley porque evidentemente

no se consigue con esta reforma veremos próximamente nuevas reformas en ese sentido que es un paso más a la dualización del sistema de sanidad en el que como he dicho en mi primera intervención por una parte irán o serán tratadas

privadas al servicio de los empresarios de las empresarias y de la patronal la salud laboral

estamos habilitando ya un sistema nuevo de comunicación electrónica entre las mutuas y nuestro sistema público de salud en concreto a través de las inspecciones medicas del departamento de salud

para sustituir a los métodos tradicionales hasta ahora utilizados que como primera medida

la recepción de las propuestas de alta en la inspección médica y la respuesta desde la inspección a las mutuas en principio hasta tenerlo en marcha trabajamos con la idea que va a servir para mantener la proporción de respuestas

pese al acortamiento legal de los plazos previstos en la ley treinta y cinco barra dos mil catorce en todo caso

las mutuas con esta nueva ley siempre pueden repetir la propuesta

por parte del sistema público de salud que no resulte satisfactoria

y así lo entendemos un traslado de nuestras competencias en el sistema público de salud

nos gusta se está trabajando actualmente en la habilitación del acceso electrónico a la historia clínica del sistema público de salud por los médicos de las direcciones provinciales del inss este acceso será limitado y solamente estará disponible para aquellos trabajadores de incapacidad temporal

y solo durante el tiempo que dure dicho episodio de incapacidad temporal y solo para el episodio afectado no se contempla dar acceso a los médicos de momento de las mutuas este departamento de salud trabaja en la línea para que sea su inspección médica quien reciba las solicitudes de autorización de las mutuas

sobre su autorización que no contemplamos retribuir en cuanto a la valoración que desde este departamento realizamos en la modificación de la ley podemos decir que la realización de pruebas diagnósticas y de tratamientos por parte de las mutuas

siempre que el paciente dé su consentimiento y el resultado esté disponible para los médicos del sistema público de salud no implican necesariamente una disminución de la calidad de la asistencia dispensada ni conculcación alguna

en este sentido la propia ley treinta y cinco barra dos mil catorce ya establece de forma nítida y leo textualmente que en ningún caso las pruebas y tratamientos supondrán

derivada de contingencias comunes ni dará lugar a la dotación de recursos destinados a esta última ez dugu ahaztu behar langileak aurretik bere

duela que el acortamiento en el plazo de respuesta por parte del sistema público de salud a las propuestas de alta de las mutuas y la posibilidad de repetir la propuesta

lo consideramos un paso a favor de la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común por las mutuas nos gusta y adoptaremos medidas para paliarlo desde el sistema público de salud en este sentido esta medida venía ya anticipada en el real decreto seiscientos veinticinco barra dos mil catorce de dieciocho de julio por el que se regulan determinados aspectos

por incapacidad temporal en definitiva el departamento de salud muestra su voluntad de seguir manteniendo la gestión de la incapacidad temporal

en el sistema público de salud desde la confianza en el rigor de trabajo de sus médicos

en este ámbito en este orden de cosas no nos parece exagerado señalar

en materia de incapacidad temporal han devaluado las funciones de los servicios públicos de salud

por contingencia común pero para nosotros lo más importante

la necesidad de abordar el traspaso del régimen económico de la seguridad social a euskadi incluyendo las mutuas en su supervisión y control creemos que esta es la mejor fórmula para construir un marco vasco de protección social el que se establezca con claridad

osakidetza no tiene intención a día de hoy como está hablado en el presupuesto de este año no hay intención de abrir una nueva unidad de resonancia magnética en el hospital de debagoiena porque considera

a día de hoy se encuentran cubiertas de forma satisfactoria gure ustez

batean nuestro apoyo a la comarca yo creo que es de sobra conocido como usted sabe hay un nuevo hospital

fue planificado en una legislatura en la que este partido también gobernaba y que después fue continuado por el partido socialista en la legislatura pasada también en la pasada legislatura concretamente desde diciembre de dos mil once se hizo un concierto con un centro de diagnóstico para la prestación de estudios de resonancia magnética

inicialmente pacientes de la osi debagoiena y la osi

resonancia magnética a día de hoy el objeto de este concierto con la contratación

eficiente la accesibilidad de las personas en la comarca debagoiena como en todos los contratos

que deben estar presentes en la prestación contratada osasun sailak

fruto de un acuerdo presupuestario con el partido socialista que compartimos y estamos seguros que

en esa comarca esto también ha permitido dedicar la unidad móvil concertada a tiempo completo la osi debagoiena si me permite y saca usted

en pocas comarcas con la población que tiene la comarca debagoiena y después de la construcción del nuevo hospital se ha mejorado tanto

tanto en su adquisición como en su mantenimiento que viene a suponer anualmente casi el diez por ciento del precio de coste el coste de las máquinas últimas que ha instalado osatek y que prestan el servicio a los pacientes de osakidetza

como ve hablamos de inversiones muy importantes que es necesario planificar para que resulten coste efectivas y que aseguren una ocupación intensiva

la inversión realizada más aún en los tiempos actuales en el año dos mil catorce se hicieron en la unidad móvil por la que usted pregunta

exploraciones en la osi alto deba y seis mil ciento cincuenta y nueve

alto urola la unidad móvil instalada ahora de forma fija en la osi debagoiena ha realizado en este primer cuatrimestre de dos mil quince

exploraciones y no es porque lo diga el consejero es un volumen de exploraciones que difícilmente a día de hoy justifica la inversión y precisa una solución más eficiente que la instalación de una resonancia fija

creo que le he entendido que osakidetza no está dispensando

pues bien es falso y usted lo sabe perfectamente ahora en el turno de respuesta me puede enumerar usted cuáles son los nuevos medicamentos que no se están dispensando o es que habla usted sin rigor alguno su pregunta concreta hoy es por qué no se están dispensando estos medicamentos pues ya le he contestado mire se están dispensando

eskerrik asko me refiero a los que aparecen en la estrategia del once de mayo que el señor zulaika ha salido también en los medios de comunicación diciendo que se están dispensando pero según la plataforma de pacientes os pacientes no están recibiendo entonces igual

no por qué no están dentro de la estrategia sino por qué no salen de la farmacia

nosotros y nosotras solo valoramos lo que ustedes dicen públicamente y lo comparamos con lo que nos dicen los pacientes o las plataformas que los agrupan

seguramente está usted de acuerdo con este grupo al afirmar que cuando las plataformas que agrupan a estos pacientes se encierran en los hospitales no lo hacen por gusto ni por fastidiar a nadie lo que ocurre es que cuando acuden a su especialista la respuesta no es la misma que las que ustedes dan públicamente o incluso en privado

al tratamiento más adecuado a su caso entre los tratamientos disponibles y sabe usted que eso no es cierto porque hoy mismo ha vuelto a emitir que los pacientes los están tratando de manera escalonada empezando por los más graves por lo tanto

como para recibir ese tratamiento sabe usted lo que nos han llegado a decir los pacientes que prefieren enfermar para llegar a una fase cuatro y así poder ser tratado con los nuevos antivirales eso es lo que nos han llegado a decir

pero según ellos dicen que no reciben mire si estoy confundida le voy a hacer una propuesta nos reunimos ustedes nosotros y la plataforma de afectados y si estoy confundida le dejo de dar la tabarra eskerrik asko

atera diren diru sareen aurkako tratamendu berri guzti guztiak en ningún caso creo que usted da la tabarra pregunta

en su derecho hace unos días apoyó usted con su presencia una rueda de prensa de algunas de las asociaciones de afectados

era un crimen contra la humanidad y que se debía tratar a todos los pacientes al mismo tiempo cosa difícil

la de emigrar a otras comunidades el próximo jueves el pleno de esta cámara

instando al departamento de salud a definir un protocolo para el uso de los nuevos antivirales protocolo que está en uso

y voy a leer literalmente a pacientes con cirrosis compensada o no compensada

y aquellos que no responden a las terapias aplicadas dicho de otra manera

a priorizar los tratamientos o sea lo que se está haciendo por si no bastara en la justificación de su iniciativa

de restrictiva y obsoleta la misma estrategia que en la rueda de prensa que avaló dijeron que era magnífica y estaba avalada por expertos y profesionales la verdad cuesta entender su postura y la de su grupo

datos desde junio de dos mil catorce hasta mayo de este año

pacientes con los nuevos medicamentos realizando un gasto de veinte millónes de euros este gasto ha ido en su mayoría

apoyos tan vehementes como los que recibe de su grupo lo que cuesta entender es que por otro lado en este tiempo han presentado ustedes mociones en ayuntamientos instando al gobierno español a intervenir las patentes

autóctonos como ve todo ello muy serio y muy coherente por lo que no para relacionarnos con las asociaciones de pacientes nos relacionamos

entendemos perfectamente la incertidumbre ante la enfermedad pero no se puede tratar a todo el mundo el mismo día

de tratar a todos los pacientes y así va a ser los datos y los hechos están ahí y son la prueba más clara de lo que estamos haciendo eskerrik asko